con la voluntad de suscitar de nuevo la atención en torno a dos dimensiones que coexisten sobre esta materia en la actualidad de un lado la confrontación de modelos económicos y sociales al igual que hemos hecho en un punto anterior y casi entiendo

modelos económicos sociales del capitalismo puedan ausentarse yo si fuera el profesor que no es el caso desde luego

son escasas y tampoco se trata de perderlas

y por otro la voluntad de hacer una apelación sincera y nos gustaría que efectiva basada en el análisis de la realidad de lo que está pasando ahora de eso que dice que nos está cayendo

e inviable estoy seguro de que lo primero la confrontación de modelos se producirá y no me engaño ni creo que les engañe si digo que soy sumamente escéptico ante la posibilidad

no obstante insistiré y entiendo que no deba parecerle mal a nadie más allá de las horas en que se reproduzca este debate por aquello de que el insistencialismo

sino que en todo caso la inventó jonan fernández y jonan fernández no es persona del desagrado

en euskal herria bildu a lo que ustedes llaman desarrollo nosotros lo llamamos desarrollismo

el desarrollo es el camino para satisfacer las necesidades reales de la ciudadanía y las demandas actuales de los vascos y las vascas no creemos que pasen por acortar

que les separa de madrid o de paris creemos en todo caso que el desarrollo pasa por asegurar una educación y sanidad pública de calidad por mantener un sector público potente que nos proteja de aquellos que cada vez aglutinan más sectores estratégicos como las telecomunicaciones la alimentación la banca la energía

y cada vez más el transporte y creemos que hay varias o por lo menos dos dimensiones que es de las que les hablaba al inicio entrémosle a los tres elementos que siempre se señalan como indispensables a la hora de abordar

el de rentabilidad social la rentabilidad medio ambiental y la rentabilidad económica

en la rentabilidad social y en la medio ambiental cualquier concepción del desarrollo no la nuestra no la de eh bildu no la bolivariana cualquiera en el mundo

como digo cualquier concepción del desarrollo no contempla de ningún modo rebasar los limites de la sostenibilidad ambiental ya ven nuevas líneas rojas

cuando hablamos de presupuestos porque cuando hablamos del tav o de la necesidad del tav estamos hablando de movilidad y no nos confundamos

salvo que aceptemos ser un pueblo nómada hasta el fin de nuestros días pero creo que nadie en esta cámara plantea algo semejante la movilidad no debe ser más que un instrumento para el desarrollo de la vida

por tanto una movilidad sin límites nunca puede ser el modelo por supuesto que desde euskal herria bildu apostamos por el transporte público colectivo y ferroviario sin duda es uno de los más sostenibles y es cierto pero se convierte

asociado a dicha demanda que es lo que de manera más grafica evidencia el tren de alta velocidad siguiendo con el tema medioambiental y ya que se empeñan en vender el tren de alta velocidad como algo verde no sé si verde heineken como decían antes me gustaría y aprovecho que está aquí la señora consejera como última responsable del ura de la agencia vasca del agua

todo lo que se produce con las obras del tren de alta velocidad nos gustaría saber y vamos a tener la oportunidad de preguntarlo para conocerlo así y ponerlo en conocimiento

saber si se han tenido en cuenta el principio de precaución y si la afección a las cuencas vertientes y ríos en las obras siguen los parámetros exigidos por la agencia vasca del agua a nosotros nos consta a día de hoy que parece ser que no a su vez también pediremos información sobre la afección a acuíferos niveles freáticos y a manantiales naturales al paso del tren

de este proyecto de este macroproyecto supongo que nadie querrá

nadie querrá que esto pase al cajón del olvido y que esta afección medioambiental no sea tenida en cuenta para

ehuneko laurogeita hamar osatzen duten bidai laburrena hain zuzen ere esa es la realidad el noventa por ciento de los desplazamientos en nuestra comunidad son desplazamientos intracomunitarios

desplazamientos cortos dentro de un país que se vértebra pueblo a pueblo no solo en las capitales que huye de la idea de euskal hiria para creer en ultra idea en una idea de pueblos y ciudades vivas

kontra azaltzen diren eragile mugimendu sozial edo sindikatuak por ejemplo la mayoría sindical vasca o el gune social que engloba también

cuando califica de escándalo y de esperpento que el ejecutivo vasco presente unos presupuestos recortados en mil ciento treinta y dos millónes de euros y al día siguiente

del tav la pregunta que nos hacíamos de forma recurrente era que no había dinero no habíamos quedado en que no había dinero

por último y en lo que tiene que ver con la rentabilidad social y medioambiental nos inquieta conocer la planificación integral de este gobierno y de quienes sostienen el proyecto del tren de alta velocidad entorno al transporte hace unos años el transporte aéreo era la solución de ahí que tengamos euskal herria llena y rodeada de aeropuertos

un poco más útiles que el de castellón pero algunos poco más

se apuesta a ciegas por el tren de alta velocidad y una vez fracasado el tren de alta velocidad o superado cuál será la siguiente obra faraónica

y entraré ahora ya con la rentabilidad económica que es el otro gran elemento capital si ya lo siento ya les he dicho que podían abandonar escaño si creían que lo sabían todo y en su caso probablemente sea así

porque es otro de los elementos que se argumentan como fundamentales para justificar la necesidad del tren de alta velocidad pues bien seguir confiando la construcción desbocada como elemento tractor económico y el presupuesto presentado por el gobierno vasco lo sigue haciendo porque incide en este sentido y además lo hace con el argumento de con la que está cayendo otra de las grandes frases del momento como si lo que está cayendo fuera un fenómeno natural o meteorológico y no algo

parece una invitación o un billete sin retorno hacia el fracaso colectivo y se hablaba antes de la responsabilidad que tenemos que tener los gobernantes con los recursos de todos no creo y además lo digo con sinceridad

está la de llevarnos a todos hacia un camino sin retorno o a un fracaso colectivo pero la

podemos ir encaminados si seguimos invirtiendo nuestros recursos en

con cemento y con vías férreas como las del tav makroazpiegituraren eraikuntza mekanismo errazena da ekonomian dirua sartzeko eta enplegua sortzeko

ante la voluntad de mantener el tramo ferroviario en gipuzkoa sino que además nos queremos postular como impulsores principales

nos gustaría en todo caso poner la vista

porque solo podemos explicarnos esta realidad si no es desde el interés por favorecer determinados volúmenes de negocio y determinados volúmenes de contratación volúmenes de contratación y estos son datos objetivos no son datos que yo me invente que tienen a sus espaldas novecientos accidentes laborales en las obras en gipuzkoa que tienen cinco muertos en las obras en gipuzkoa y que tienen según palabras de la propia euskal

esa es la realidad de esa infraestructura de la que tanto presumimos pero además probablemente favorecer al lobby constructor favorece también que sigamos

sobre la necesidad de reformar la gobernanza para hacer una buena gobernanza pues bien un modelo que favorece a las constructoras y hablaba de oscuros intereses

interpelación es sospechoso cuando menos para algunos que algunas de las constructoras que están participando en el trazado del tren de alta velocidad

ruz y el juez gómez bermúdez si no me equivoco por su vinculación

no sé si reales o no pero en los papeles de bárcenas tienen nombres y apellidos y se pueden decir

pero ese lobby alimenta como señalaba la precariedad laboral y el abuso ilegal de la subcontratación

y lo dice el presidente de seopan que es la patronal de la construcción dice que no es

ningún ave tiene sentido señala señala además algo que ya conocíamos y que ya se ha dicho en esta cámara

que tenemos dos mil ciento cuarenta y cuatro kilómetros de red solo nos supera china y japón que para quien quiera entender ante un volumen geográfico y ante un volumen poblacional como el que mantienen unos y otros respecto a nosotros

han visto durante mucho tiempo en esta realidad y termina señalando

aquí no tiene sentido y termina con una frase que es cuando menos curiosa y es curiosa que la digan ellos también los políticos no te hacen ni caso

la apuesta por el tren de alta velocidad por lo anteriormente expuesto pero mucho menos ante la realidad de que a medio plazo y me gustaría que en esta cámara alguno de los que luego vaya a defender el tren de alta velocidad sea capaz de señalar una fecha para que quede

como digo que pueda salir a señalarme en qué fecha se pondrá en arranque el tren de alta velocidad en qué fecha recogerá a su primer viajero porque no hay realidad que ampare esas fechas

porque en parís porque en francia tampoco hay

conocerán señala que cree que no se va a realizar y lo dice el alcalde de hendaya podría ser el dos mil veinticinco una fecha posible atrévanse a decir una fecha y decirles a los ciudadanos ya que gobernamos sus dineros y no queremos malgastarlos

más los mil setenta y ocho que lleva el gobierno vasco invertidos en el tramo de gipuzkoa aunque luego vía cupo señale su recuperación

por lo que también se señala y no nos vale como respuesta que la financiación corre a cargo del estado español ya que nunca se invierte nada

menos aún cuando se baraja más adelanto presupuestario por parte del gobierno vasco para araba y bizkaia como es señalado los problemas en la negociación del cupo

o incluso hoy conocemos también que hay una deuda expresada por miembros del tribunal vasco de cuentas públicos ninguno elegido

de seguir ninguna estrategia connivente con nuestra posición de ciento setenta y ocho millónes de euros que en teoría nos debe el gobierno por las obras que el gobierno vasco ha acometido en el tren de alta velocidad

seguir apostando por adelantos para esta infraestructura con esto que estamos contando nos parece a nosotros sencillamente temerario nuestro horizonte pasa por poder gestionar íntegramente nuestros presupuestos

un modelo económico y social que permita que por ejemplo no tengamos que caer dentro de cuatro meses aquí en cuenta

la renta de garantía de ingresos o para las aes ha sido insuficiente dado que se ha

obviando que el año pasado se tuvieron que destinar setenta millónes suplementarios porque no llegaba con lo presupuestado

sí muchas gracias presidenta voy a ser muy breve porque a estas horas para un grupo parlamentario que tiene un solo escaño lógicamente estos plenos son excesivamente largos y uno no puede entrar al trapo de todo lo que

iniciativas que pueden ser consideradas interesantes como esta por lo tanto voy a ser muy breve únicamente digo que eh bildu ha presentado una iniciativa que nosotros consideramos inasumible e irrealizable

con el señor óscar matute en todo caso en fin

me remitiré a lo que otros portavoces puedan decir en todo caso

de totalidad no estamos de acuerdo con la propuesta original creo que esta enmienda de totalidad planteada por el grupo upyd en fin está básicamente recogida en la enmienda transaccional y por lo tanto lo que nos queda es votar a favor de esa enmienda

extraordinaria del tren de alta velocidad no voy a hacer una defensa

si echamos la vista atrás creo que se han hecho las cosas demasiado mal

no tienen vuelta atrás y por lo tanto en fin

o pretender que determinadas obras que ya estén ejecutadas se paralicen o se olviden pues en nuestra opinión solamente puede ser considerado como

muchas de las cosas que se han hecho en relación con el tren de alta velocidad y el ave en el conjunto de españa

se habrían hecho de otra manera y esta es la opinión de upyd a día de hoy y un punto más y de manera muy breve

que este tipo de obras puedan sufrir retrasos no nos parecen ningún tipo de dramas dadas las estrecheces presupuestarias de este gobierno y del gobierno de españa y de todos los gobiernos no nos parece ningún drama que este tipo de obras puedan sufrir determinados

lo más grave es que puedan sufrir retrasos las políticas sociales el impulso a la actividad económica o a la promoción del empleo y todas aquellas políticas que sirvan para salir de la crisis en fin esto es lo que yo básicamente quería decir

la transaccional e insisto en que para nosotros no es en absoluto

pueda sufrir algún tipo de retraso como consecuencia de la situación económica en la que nos encontramos pero paralizar determinadas obras que ya están en marcha nos parece irrealizable nos parece inasumible y por eso votaremos a favor de esa enmienda transaccional que efectivamente nosotros también hemos firmado

muchas gracias señora presidenta señora consejera compañeros parlamentarios y parlamentarias el tren de alta velocidad avanza es un proyecto estratégico para euskadi un proyecto que nos sitúa en el mapa de la modernidad del trasporte

que interconecta nuestras capitales nos conecta con el resto de españa europa y es una infraestructura irrenunciable para nuestra articulación como una sociedad del siglo veintiuno

es una actuación que afecta por una parte a la calidad del día a día de los ciudadanos y por otra al futuro

y mejorar la competitividad de nuestra economía y nuestras empresas

para defender como prioridad para la sociedad vasca continuar apostando por la construcción del tren de alta velocidad no solo eso los socialistas vascos consideramos que sin duda que la y vasca ha sido la infraestructura más importante

de euskadi un tren que aunque eh bildu diga que no va a ninguna parte es una pieza clave del ferrocarril de alta velocidad del suroeste de europa un tren englobado

organizado alrededor de una estrategia de intermodalidad señor matute usted está diciendo en su intervención

el catedrático de econometría de la upv francisco javier fernández estudió el impacto económico en euskadi de la nueva red ferroviaria vasca y estima que la construcción del tren de alta velocidad supone un impacto total

mientras que su posterior puesta en marcha y explotación supondrá un incremento de doscientos trece millónes de euros al año

a tiempo completo durante quince años dos mil ochocientos directos mil novecientos indirectos

y mantendrá mil novecientos veintidós empleos desde la puesta en marcha y explotación

asimismo el señor fernández considera que reduciría diariamente en varios miles el número de desplazamientos por carretera lo que supone su análisis supondría unos beneficios sociales y medioambientales

y medioambiental ahí tiene la prueba y no lo dice el partido socialista lo dice un catedrático de la universidad del país vasco ustedes decían en su programa electoral

que se priorizaría aquellas infraestructuras de transporte que cohesionen la comunidad autónoma del país vasco eso es lo que hace el tren de alta velocidad cohesionar euskadi

también decían que la gestión de su política de inversión en infraestructuras para el transporte se basaría en el principio de rentabilidad social los números que le acabo de decir

pero bueno ya sabemos que lo que no quieren ver pues no lo ven tenemos que continuar apostando por el tren de alta velocidad como ustedes saben al gobierno vasco

y le recuerdo que en el mandato del lehendakari ibarretxe solo se puso en marcha

tres coma seis por ciento de la encomienda de gestión y nadie podrá negar nunca que el avance a alta velocidad nunca mejor dicho del ramal guipuzcoano se haya realizado en la pasada legislatura con el lehendakari lópez en estos momentos

es decir diecisiete tramos están en ejecución o finalizados es decir

el setenta y siete coma seis por ciento del trazado del ramal están ya en proceso de construcción o finalización

los accesos a san sebastián e irún y la conexión con la frontera francesa por parte del ministerio de fomento

continuara con ese ritmo no tendríamos ninguna dificultad para confirmar nuestra capacidad para culminar la encomienda en el año dos mil dieciséis como la sociedad vasca espera y desea porque le recuerdo que en campaña electoral el partido nacionalista vasco decía que iban a impulsar el proceso de ejecución de la y vasca de conformidad con los plazos previstos

que ha fijado en dos mil dieciocho el momento en el que en el mejor de los casos

y no nos sirve que nos diga la señora oregi que el ramal guipuzcoano tiene la fecha de finalización en verano del dos mil dieciséis pero que el ministerio dice que una vez terminada la obra civil luego viene la superestructura condicionamiento de las vías

esto no es lo que necesita la sociedad vasca no es lo que nos está demandando necesitamos que el gobierno vasco continúe apostando por el tren de alta velocidad en todos sus tramos y en cuando a los tramos de bizkaia y álava que competen al ministerio de fomento por medio de adif

que el gobierno vasco realice las gestiones oportunas y necesarias ante el gobierno de españa para que avance en paralelo a las gestiones del propio gobierno vasco en gipuzkoa

por la prensa que tienen intención de asumir la gestión y el coste de las obras en dichos tramos para que luego de descuenten

sistema que durante la pasada legislatura el gobierno socialista ha aplicado en tramos guipuzcoanos y que se puede extender al resto de los territorios sin ningún problema pero siempre con un fin el fin de que los trabajos lleguen a continuar el calendario previsto

llega a euskadi en dos mil dieciséis señora consejera el señor lehendakari no se debe dormir en los laureles y conformarse con que el gobierno central nos diga que

y prioritaria no es suficiente necesitamos hechos la sociedad vasca necesita hechos debemos obtener también de la ministra pastor la garantía que en los plazos más breves posibles

así como con el corredor navarro y la frontera francesa el grupo socialistas

de que la coyuntura económica por la que atravesamos no es la mejor pero también es verdad que esperamos que la voluntad política del señor lehendakari y de usted señora consejera

y no solo los presupuestos sino también incluso más importante en la gestión que ustedes realicen muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

en la reciente reunión celebrada en madrid entre la consejera de política y medios de transportes y la ministra del ramo

uno el relativo a lo que propiamente son las obras de lo que llama el tren de alta velocidad y dos el que se refiere a la priorización de los gastos en el ejercicio presupuestario dos mil trece

matute usted entiende que la prioridad de este gobierno no es la garantía de los servicios públicos sino la construcción del tren de alta velocidad siento decirle que no acierta en ningún modo

tales como sanidad educación o los servicios sociales basta con efectuar un rápido vistazo al proyecto de presupuestos presentado en la cámara

un adelanto del debate presupuestario correspondiente al ejercicio del dos mil trece y al respecto debo decirle que

la señora pinedo ha dicho aquí literalmente algo así como hoy no es el momento del debate presupuestario creo que ha dicho usted esta mañana creo que ha dicho eso no efectivamente lo que usted como digo propone es un adelanto de ese debate

el discutir sobre la paralización de los créditos presupuestarios para este año

inicialmente a la propuesta recogida en la transaccional firmada por el grupo socialista y con upyd

a las políticas sociales al impulso económico y a la promoción del empleo es decir que en los presupuestos de gastos del importe máximo que se pone a disposición del gobierno

aunque nosotros preferimos llamarlo inversión social porque si bien estos gastos no se justifican en carácter económico productivo sí lo hace en valores de solidaridad

que también son elementos para la competitividad el proyecto

proponen deben presentar los números las cantidades en los que apoyan estas propuestas la pretensión de su grupo de que no se invierta en las obras de lo que llaman el tren de alta velocidad

y además les sirve de paso para no definir cuáles son sus prioridades y preferencias su modelo de sociedad en el actual escenario económico porque señores de bildu la incidencia de la financiación de las obras del tren de alta velocidad en el techo de gasto para la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma vasca es

vamos ahora con esta segunda parte de su iniciativa la que se refiere a lo que supone la infraestructura de lo que usted llama el tren de alta velocidad que no es propiamente el tren de alta velocidad sino que es una infraestructura

en este caso sí se trata de una inversión que se puede cuantificar en términos de rentabilidad económica o productiva debo decirle que nos ha defraudado en su intervención porque pensábamos que iba a intentar demostrar a su juicio la escasa o nula rentabilidad de esta inversión

señor matute el impacto económico de las inversiones logísticas para el crecimiento y el empleo se considera fundamental en una sociedad europea como la nuestra así se

mire usted desde la propia administración se contabiliza la consecución de treinta y seis empleos directos por cada millón de euros de gasto público en este concepto ya se ha hecho referencia

un estudio realizado específicamente para esta infraestructura en la que considera

mil novecientos veintidós empleos duraderos durante la puesta en marcha y explotación de la red

un retorno fiscal cercano al sesenta por ciento es decir de cada cien euros invertidos la comunidad autónoma vasca recupera

desde diversos organismos internacionales pasando por la patronal que aunque

de su devoción institutos independientes se interpreta que la mejora de infraestructuras es una inyección directa

la logística supera ya al capítulo de gastos de personal día a día observamos la ventaja competitiva que supone la calidad de las infraestructuras de transporte la semana pasada lo hemos visto en esta cámara con motivo de la comparecencia en comisión

ustedes entienden que destinar recursos públicos a la construcción del tav es un dispendio nosotros entendemos que hay que racionalizar el gasto público hasta el último euro hoy en día máxime en las actuales circunstancias como le digo y que hay que revisar las prioridades por eso

en las actuales circunstancias nuestro orden sería el siguiente primero capital humano

social sanidad y educación después capital tecnológico

pero esta priorización no quiere decir que abandonemos alguno de estos apartados de estos capitales vamos a mantener unos niveles razonables de inversión

infraestructura que no es un capricho de esta comunidad sino que forma parte como ya se ha dicho de una red transeuropea y cuya apuesta en servicio y utilización supondrá

finalmente permítame realizar una reflexión sobre el carácter de los créditos con los que la comunidad autónoma del país vasco financia

no realiza ninguna aportación de los créditos que se ponen a su disposición

la financiación de estas obras no minoran no reduce un solo

para decidir a qué se destinan los gastos del presupuesto se trata de una obra de interés general del estado y de un corredor transeuropeo

el coste de las obras realizadas por el gobierno vasco correspondiente al ramal bergara irun se descuenta del pago del cupo al estado y

matute que el cupo es el pago que anualmente realiza el país vasco al gobierno central para financiar las competencias que este desarrolla por lo que se llaman competencias no asumidas

como es el caso del gasto correspondiente al tren de alta velocidad y estas obras no tienen como digo

contenido en los presupuestos que como consecuencia de un convenio entre el gobierno

lehendakari ibarretxe se financia mediante recursos concretos que corresponden al estado

gastos que en caso de no realizarse como ustedes proponen no pueden recibirse y deben de ser objeto de reintegro al estado es decir que los recursos gestionados por el gobierno vasco para la construcción del tav corresponden al estado y no pueden destinarse a otra cosa

y nos pagasen contra le presentación de facturas lo que tenemos hacer es presentar las facturas correspondientes

no obstante estamos preocupados respecto de la parte que corresponde al estado

hemos propuesto que el gobierno vasco realice con el ministerio de fomento las gestiones oportunas la misma fórmula de colaboración una encomienda de gestión entre

por eso proponemos que el gobierno vasco insisto realice estas gestiones

con la meseta con nafarroa o con iparralde y para ello hemos alcanzado un acuerdo con el grupo socialista y con upyd para el que solicitamos la aprobación de los grupos no enmendantes

mila esker presidente andrea señorías voy a intentar ser tan breve como el señor matute y comenzaré diciendo que

el esfuerzo además muy bien realizado de aportar información de aportar datos lo que tengo que

usted no sabe que llevamos tanto tiempo debatiendo sobre esto en esta cámara tantas veces

tantas vueltas que también volvemos a asistir hoy a un nuevo día de la marmota

cuando el señor matute pertenecía a otra formación política también salía a esta tribuna con los mismos argumentos han pasado años se ha

se ha evolucionado también pero algunos se quedan en el pasado y algunos se anclan a pesar

a pesar del desarrollo de los tiempos se quedan anclados en mensajes no sé si bolivarianos

muy caducados y es cierto que hablamos de una infraestructura que moderniza euskadi lo que no es menos cierto también

es cierto que hablamos de una infraestructura que nos va a hacer ser más competitivos en un mundo cada vez

y cada vez más difícil pero es cierto que hay algunos que no creen en que debamos de ser más competitivos y es cierto también que nos va a hacer ser una comunidad que va progresar que nuestros ciudadanos van a progresar

en el progreso de euskadi y es cierto también y yo creo que aquí está en parte la madre del cordero si me permite esta expresión que es una infraestructura que nos va a conecta también con nuestro entrono

con europa y es una infraestructura que nos va a conectar también que nos va a hacer más permeables también al resto de españa

que tampoco les gusta y usted verá señor matute cómo va a poder disfrutar y lo bien que le va a venir utilizar el tren de alta velocidad para viajar por españa con mucha más

si es que sale de euskadi y no es menos cierto también no es menos cierto también que es una infraestructura

y aquí dentro en parte del absurdo en el que existimos esta tarde

tiene todo el trazado guipuzcoano o en obra o adjudicado el que compete al gobierno vasco

la ejecución y sorprendentemente hay un grupo parlamentario

la pregunta que yo me hago y que seguro que se hace algún ciudadano que nos esté viendo es

y les hiciéramos caso qué hacemos con el trazado con la infraestructura que ya está construida qué sucede qué hacemos con

ya invertidos en una infraestructura los dejamos ahí tirados esa es la propuesta de eh bildu sinceramente eso es lo que usted

porque aquí se ha invertido dinero dinero de todos de todos los ciudadanos no solo de los ciudadanos vascos del conjunto de los ciudadanos españoles que con su solidaridad nos están ayudando a que desarrollemos una infraestructura vital para el desarrollo de euskadi y es una realidad objetiva que por mucho que algunos se empeñen

es como se la estamos contando

usted me miraba yo no lo sé todo se lo puedo asegurar y soy plenamente consciente de no saberlo todo lo que pasa es que

porque la verborrea puede estar muy bien para un mitin pero en una cámara esa verborrea infinita no enseña nada entonces usted no se tiene que molestar

si nos diera argumentos quizás podría convencernos de alguna manera pero no

que es muy legítimo es muy legítimo que alguien quiera utilizar la tribuna del parlamento vasco y esta institución

a hacer un mitin porque ustedes saben que la y vasca se va a hacer

espero que sea cuanto antes espero que sea en el dos mil dieciséis

lo que si le aseguro es que se va a hacer y esta infraestructura ha superado muchas dificultades muchísimas ha superado

fundamental y esta infraestructura ha superado

no sé si les hace gracia pero les puedo asegurar que por ejemplo a la familia de inaxio uria no les hace ni la más mínima gracia

desde luego a la familia no y a la inmensa mayoría de los que estamos aquí sentados que tenemos algo de dignidad tampoco nos hace ninguna gracia y aunque sea solo por esas dos cosas por esas dos cosas porque es buena para euskadi

le aseguro y no le quepa ninguna duda que se va a construir y es más usted la utilizará

andrea yo no he dicho que iba a ser breve y ahora tampoco lo seré hasta que el tiempo se agote

a usted usted dice que nos mantenemos anclados en el pasado y que defendemos o que este portavoz defiende las mismas tesis que antes

ahora está usted también anclado en el pasado por defender lo mismo no usted está

nos habla de la imposibilidad de arrancar con el tav

paralizaron el proyecto de tren de alta velocidad que unía amsterdam con el ruhr con mucho más volumen poblacional que este no se cayó el mundo

cualquier caso habla de qué hacer con lo que ya hay iniciado tendrían que planteárselo en cualquier caso ustedes que han sido tan firmes defensores pero les diría que

tapar todo el agujero que ya había iniciado algo harían

mire la hemeroteca si quiere citar a inaxio uria y si quiere citar la posición que este portavoz tuvo en ese debate

señalarnos cómo acceder a la misma porque yo ya tuve una posición bastante clara con eso que usted ahora parece que duda si está en los debates de forma presencial y desde luego

que le está hablando planteaba el representante del partido socialista una serie de cuestiones y planteaba como talismán mágico el informe del señor fernández

podría usted ver que en esta cámara se han sacado en muchas otras ocasiones por este parlamentario y por otros

por muchos más catedráticos universitarios que el propio señor fernández que actúa a instancias y hace bien poquito tiempo de una parte en este caso del gobierno mientras que toda esa gente y la persona de referencia puede ser roberto bermejo para que le ayude a localizarlo

supongo supongo que crear cuatro centrales nucleares en este país

también hay quien decía que estaríamos comiendo berzas cierto es si no se construía la central de lemoiz pero es que a veces los tiempos pasan por encima de las verdades absolutas

y le señalaba le señalaba un par de cuestiones ya que me dice que mantengamos niveles de información alto sobre lo que en esta cámara señalamos

que respecto al ritmo que usted señala como ritmo de finalización de la obra que es el dos mil dieciséis usted cae en la imposibilidad

voluntad de mentir porque usted sabrá mejor que yo porque tiene más relación directa con el que ha sido consejero de la que yo tengo en la anterior legislatura que hay tramos adjudicados por el partido socialista de euskadi que no han empezado y que tiene un plazo previsto de ejecución

eche cuentas señor zaballos y mire por ejemplo en el tramo zizurkil andoain y dígame

pero le digo más ya que me habla del dos mil dieciséis y me dice que ese es un plazo factible de finalización explíqueme

de seis kilómetros y por tanto con mayor plazo de ejecución no cuenta todavía ni siquiera con proyecto y se estima que dure como mínimo cinco años y medio vuelva a hacer cuentas señor zaballos y dígame que sale el dos mil dieciséis porque a lo mejor tenemos que retornar todos a la primaria para aprender a sumar nuevamente y respecto

no nos la hemos sacado de la chistera mi oposición al tren de alta velocidad ha sido señalada en esta cámara en multitud de ocasiones la de la izquierda abertzale también la de aralar en la anterior legislatura también señor aguirre que sí que es así no se ponga

pero como le decía la oposición ha sido siempre por tanto no es una coartada lo que tengamos que hacer con los presupuestos tendrá que ver con lo que usted dice que es el núcleo de la política social porque es cierto que yo no tengo ninguna simpatía con confebask por no tenerla no la tengo ni con confebask ni con adegi que anda

yo no sé no voy a presumir ni a prejuzgar cuál es la postura que ustedes mantienen en torno a confebask y a adegi pero en cualquier caso sí hay sí acierta y en eso no puedo

le voy a poner encima de la mesa una cuestión y es la misma pregunta que he hecho antes y no me ha respondido

una cantidad esa cantidad es la misma que aparece en el dos mil trece a la cantidad del dos mil doce el gobierno del partido socialista tuvo que hacer una provisión de setenta millónes de euros en mayo porque ya no llegaba pero ustedes

aún así siguen hablando de que es el presupuesto más social las dificultades para aprobar el presupuesto que puedan tener

presidente andrea en relación a la fecha de finalización que me pregunta el señor matute no nosotros no estamos en el gobierno y le recuerdo que el gobierno quien lo ostenta el partido nacionalista vasco y lo que este parlamentario ha dicho en esta sede es que nosotros exigimos el cumplimiento de la encomienda de gestión de dos mil dieciséis y lo de dos mil dieciséis no es algo que he dicho yo sino que lo ha dicho la propia consejera y se lo acabo de decir en mi primera intervención

del ramal de gipuzkoa estará finalizado en dos mil dieciséis o sea no es algo que lo digo yo sino lo dice la propia consejera

no he mencionado en su moción su proposición no de ley dice literalmente el gobierno vasco y el ministerio de fomento han acordado dar

a pesar de que en estos tiempos de crisis las prioridades presupuestarias de las instituciones públicas deberían estar centradas en garantizar los servicios públicos

que la consecuencia de la construcción del tren de alta velocidad es que se produzcan recortes en los servicios públicos y no es verdad aquí no se da

reacción y tanto usted como yo lo sabe que eso no es así

que hemos tenido un lehendakari que ha apostado por el tren de alta velocidad y ha mantenido unos servicios públicos de calidad

tienen sobre las grandes infraestructuras de euskadi como es el tren de alta velocidad

que no nos sorprende como ha dicho el señor semper porque es el posicionamiento que ha tenido siempre la izquierda abertzale para paralizar las grandes obras y si no mire lo que ha sucedido con la autovía de leizaran

que de la cual la izquierda abertzale hizo una bandera reivindicativa e intentaron dividir a la ciudadanía

que una vez inaugurada tanto los detractores

están disfrutando de las ventajas ventajas que como ya he dicho en los datos del informe del estudio de la universidad que como usted dice hay muchos estudios a ustedes les convienen unos

y eso es lo que va a suceder se suba eh bildu al tren de alta velocidad o no se suba

no dude en ningún momento que el grupo socialistas vascos seremos los primeros que estemos

tal y como se merece la sociedad vasca y le voy a hacer un apunte tanto que ha hablado usted de las aes

gobernado por ustedes si eso en esta época de crisis es pensar por los ciudadanos vascos

debates sociales en fin una guasa en este tipo de infraestructuras llevan un periodo de maduración como usted bien sabe que es el tiempo que transcurre desde que se toma la decisión hasta que efectivamente se pone en práctica

este debate se ha producido y está plasmado se ha producido con motivo de la tramitación

se ha elaborado específicamente un plan territorial sectorial etcétera

debatido y decidido socialmente eso está

que si ha habido y que diga que no ha habido debate cuando alguno de los partidos que componen la coalición

siguiendo con los aspectos de rentabilidad social

yo creo que señor matute nos falta perspectiva temporal seguramente

ciento cincuenta años que se construyó la primera red que unía bilbao con vitoria para ir a madrid etcétera y hacia europa

en sus como discurren por entorno metropolitano son redes del metro son redes del metro señor matute eso lo sabe usted de manera que insisto meta en su variable

histórica de la rentabilidad social de ese tipo de infraestructura sobre

que en la ejecución de las obras que ha hecho referencia que están contaminando los ríos arroyos

que funciona que funciona otra cosa es que se produzcan eventos y

lo sabe perfectamente no obstante a ustedes que están anclados permanentemente en el no y a los enemigos del hormigón cabe recordarles como bien sabe el señor maeztu que este asunto lo hemos discutido sí sí señor maeztu sí a usted me remito que el cincuenta por ciento de las emisiones de

de los transportes y las edificaciones por lo que cualquier mejora en su funcionamiento supone un importante avance en la lucha contra el cambio climático de la que usted es tan abanderado

los coches para el transporte de personas y mercancías de las carreteras por el ferrocarril contribuimos de manera muy importante a la reducción de los efectos del cambio climático señor maeztu

respecto también a la política ambiental decirles que hace unos años existía un documento que se llamaba libro blanco de eta que decía que para ser independientes había que tener autonomía energética

en fin parece que se olvidan de ello una pequeña digamos contradicción otra más que tienen que superar y finalmente decirle

que confunde consejeros y fechas porque el que fijó la fecha del año dos mil dieciséis fue el señor arriola fue la señora oregi la que dijo que nunca antes del dos mil dieciocho y nada más insistir de nuevo en la postura de solicitar al grupo no enmendantes el apoyo a la

también yo creo que hay que reconocer también la contribución del señor matute

un gobierno que comenzara la construcción de la y vasca que fue el gobierno de ibarretxe también al señor urizar que con pasión ustedes defendieron

de eusko alkartasuna que ahora están en bildu hicieron posible la existencia de un gobierno que

que ustedes pasen también a los anales de la historia vasca como personas que han contribuido activamente a la construcción de la y vasca y señor matute hablaba usted de demagogia

un argumento solo usted ha dicho que ese dinero además viene puesto negro sobre blanco que no se destine a la construcción de la y vasca que se destine a otras cosas usted sabe debería de saber que eso es metafísicamente imposible porque ese dinero si no se consignara para la construcción de la y vasca el gobierno central

por lo tanto o demuestra usted en su iniciativa un desconocimiento

o una demagogia que es más difícilmente corregible y para terminar afortunadamente la mayoría social y política vasca está a favor de la y vasca afortunadamente que es la que está representada

afortunadamente la mayoría política y social de euskadi está afortunadamente a favor del progreso del desarrollo y de la modernización